muchas gracias señora presidenta lo primero alegrarme por el consenso alcanzado

el parlamentario de upyd pero me alegro que el resto de los miembros votemos a favor de la proposición no de ley señor sémper yo estoy con usted

porque está en tema de vertebración estamos muy por detrás de bizkaia y de álava y creo que tenemos que hacer esa apuesta y el metro donostialdea es ahí donde va

que aquí en esta cámara aprobamos proposiciones no de ley

pero que hay que tener la consignación presupuestaria pues espero que usted también tenga en cuenta lo mismo y hable con el señor rajoy

no venga usted aquí a criticar al partido nacionalista vasco

cuando usted está gobernando en madrid por lo tanto que tenga en cuenta el nudo de bergara algo necesario para la y vasca señora vaquero

que hace once meses que yo registré esta proposición no de ley y que no se ha debatido

atemporal es decir no tienen fecha fíjese que tiene una actualidad ahora en estos momentos

la pasante ferroviaria que el gobierno ha presentado hace una semana

fíjese que de actualidad está esta proposición no de ley pero no pretenda

la proposición no de ley pero que no lo he traído aquí a debatir es porque no nos interesa le recuerdo que el partido socialista

del metro donostialdea cosa que el partido nacionalista sí ustedes en su programa electoral contemplabais el metro donostialdea el señor urkullu con eneko goia se paseaba por san sebastián vendiendo que lo iban a continuar haciendo pero cuando entraron en el gobierno

por lo tanto ustedes son los que se han bajado y ahora un año después se han vuelto a subir por lo tanto

porque el proyecto va a costar ciento sesenta y cinco millónes y la diferencia son simplemente quince

estudios nuevos que se han hecho proyectos a lo mejor incluso podíamos ya tener esos quince millónes pero bueno habla usted de alza

que esto ya venía del lehendakari e ibarretxe el metro donostialdea y ustedes erre que erre con el capricho del señor gasco y el señor arriola el lehendakari ibarretxe

por lo tanto ustedes vienen a criticar la gestión del gobierno socialista con alza cuando el gobierno del pnv del señor ibarretxe y la señora lópez de guereñu no lo contemplaba esta parada

poderles dar la oportunidad de montarse en el metro donostialdea por lo tanto lecciones pocas el partido socialista con esta proposición no de ley

el primer punto de la proposición no de ley es una enmienda que el partido nacionalista vasco presentó en el ayuntamiento de san sebastián y que fue votada por el pnv

con el voto contrario del pp y del partido socialista porque el pp y el partido socialista reclamaban la exigencia al gobierno de que como no se posicionaban a favor de la pasante ferroviaria

y por lo tanto como vemos que la voluntad del gobierno es seguir por la pasante no hemos planteado el tema del sistema tranviario

es tener en cuenta al partido socialista que está allí en la oposición me sorprende que me diga esto usted lleva en política bastante tiempo ha estado en el ayuntamiento de hernani ha estado en la diputación ha estado en el parlamento ahora mismo aquí

acuerdos que lleva eh bildu con otras formaciones son válidos y los que llega el partido socialista con el partido nacionalista vasco no lo son

yo claro que quiero escuchar al ayuntamiento de san sebastián siempre no que cuando el ayuntamiento de san sebastián o el pleno del ayuntamiento de san sebastián dice o decide algo que no le gusta al señor alcalde o a eh bildu

gracias señora presidenta señor zaballos usted tiene mucho más nivel que para hacer

porque lo que ha hecho ha sido politiqueo y que usted no lo necesita hacer no lo necesita mire

le llevará al congreso de los diputados donde tendrá oportunidad de hacer oposición al gobierno de españa pero le tengo que recordar que aquí estamos para controlar la acción del gobierno vasco

para debatir y para reflexionar intentando que sea constructivo y que sea útil sobre las cuestiones sobre las que podemos tomar decisiones en esta cámara y las que puede tomar decisiones este gobierno yo entiendo que el partido socialista tiene una obsesión que es utilizar esta cámara no para posicionarse sobre los temas sobre los que se puede posicionar esta cámara sino para hacer oposición en otros lugares allá ustedes pero yo creo que usted tiene capacidad

con más altura y es verdad señor zaballos si no hay consignación presupuestaria los acuerdos a los que se llegan son papel mojado pero es que esto no me lo estoy inventando sino que esto es una realidad y usted acusaba también al partido nacionalista vasco que me parece sorprendente y en parte

les acusaba de que no se han subido nunca al tren del metro

usted que es casi tan joven como yo recordará quizás si busca en la hemeroteca lo que decía el señor odón elorza

nos llamaron de todo el señor gasco hoy un converso

de donostialdea entonces se reía de la propuesta del partido popular en el ayuntamiento de san sebastián para construir un metro de san sebastián para toda nuestra aldea

a la limón juntos gobernando en san sebastián se mofaron de la propuesta de construir un metro en san sebastián todo el mundo tiene derecho a cambiar

eso es cierto pero les costo mucho tiempo señor zaballos

en otro escenario si ese tiempo hubiera sido más corto porque qué sucede

es cuando se empezó en este parlamento también a reflexionar sobre la movilidad y sobre las infraestructuras de transportes en los territorios históricos y en las capitales de provincia

lo que sucede es que en algunos lugares se tomaron decisiones se llegaron a acuerdos en bizkaia en bilbao y hoy el mapa

y la proyección a futuro es una pero no es fruto

sino fue de la talla de la altura y de la capacidad de llegar a acuerdo entre las diferentes formaciones políticas

proyectando la ampliación del metro hay nuevas líneas hasta bildu propone y quiere la línea tres del metro eso sucede en bizkaia

quién a gobernado en gipuzkoa el partido nacionalista vasco y ustedes cuál es el mapa hoy la foto fija del transporte

mejorado se lo reconozco en la última legislatura en la que ustedes gobernaron pero lamentable

sobre si la pasante sí la pasante no sobre si es faraónico

y el señor ernesto gasco no se nos cae la cara de vergüenza no hay más que ver hoy

que aglutina el ochenta por ciento de la población guipuzcoana las inmensas y evidentes carencias que tiene gipuzkoa hoy día todavía

en materia de transporte público en este caso por ferrocarril y eso por qué es porque no ha habido talla política no ha habido capacidad de consenso

de faraónica las inversiones que hoy con quince veinte millónes menos planteados que luego efectivamente estoy con usted llegará al mismo presupuesto

y así prest dago pero no avanzamos

de la metáfora sigue perdiendo el tren yo ya creo que ya basta de preguntas y ya basta de acuerdos que están muy bien

hace falta dinero y voluntad política demostrada con hechos porque en el mejor de los casos lamentablemente

yo creo que un poquito de vergüenza nos tendría que dar muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria vaquero andrea zurea da hitza

lo que es atemporal y no tiene límite en el tiempo es la gestión que ha hecho el partido socialista en el llamado metro donostialdea es decir se inician las obras sin consignación presupuestaria y yavendrá otro a terminarlas si es que viene eso es atemporalidad y falta de rigor en la ejecución de una obra y el ejemplo lo tenemos en loiola y lo único que tiene que hacer es pasearse por el barrio para ver

cómo está la situación de las obras nuestro programa electoral es verdad que decía que

estamos a favor de la pasante ferroviaria pero evidentemente no la que finalmente

el partido socialista y la que se tuvieron que resolver dos de los contratos ya licitados y voy a volver a recordar por qué no no es la misma es un nuevo proyecto de pasante

por qué se tuvo que resolver primero porque las obras no disponían de financiación suficiente para su ejecución la distribución de las anualidades para el dos mil trece

ejecutarse así hubiesen generado unos sobrecostes importantes incumplimiento legal conforme a lo preceptado en la ley treinta y nueve barra dos mil tres del sector ferroviario

la no disposición de autorizaciones municipales y del ministerio de medio ambiente alteraba las condiciones

la alteración de las condiciones de licitación y adjudicación señaladas hubiesen motivado una reclamación económica importante

a una indemnización económica de las seis tres hubieran tenido repercusión económica por lo tanto no hubieran sido los ciento ochenta y nueve millónes de euros que con los que estaba previsto que se concluyera la obra sino que muchos más sino muchos más

muchos más de lo que va a costar resolver los contratos es un nuevo proyecto que tendrá que ser estudiado y debatido que tiene cuatro estaciones no cinco que va a costar ciento sesenta y cinco millónes de euros y no a saber cuánto hubiera costado su proyecto eta

ongi etorriak el derecho muchas veces nos resulta

hay un concepto de derecho muy expresivo me refiero a la probatio diabolica el término apela a una prueba que

consiste en que en vez de algo que sucedió el interpelado deberá demostrar algo que nunca ha sucedido se aplica cuando en vez de presumírsele su inocencia el acusado deberá probarla o dicho de otra manera

deberá su defensa aportar pruebas suficientes para confirmar su inocencia la probatio diabolica también llamada prueba inquisitorial rompe con la lógica del estado de derecho de un estado democrático por la cual la carga de la prueba corresponde a quien pretende evidenciar la existencia

eta elkarbizitzaren kontrako eraso bat así pues este procedimiento ha supuesto una flagrante ruptura

del principio de legalidad del principio de proporcionalidad

del principio de presunción de inocencia del principio de mínima intervención del derecho penal o ultima ratio ruptura de principios que además también auguran la ruptura del estado de derecho

se puede ya reconocer como tal es por eso que como se dice en algunas de las enmiendas que hoy se han presentado no estamos hablando del respeto de una sentencia como emanación de una justicia democrática de un estado de derecho sentencia que se debe o se puede acríticamente como un auto de fe nos estamos refiriendo a otra cosa porque no es posible abanderarse en las separación de poderes cuando esta se está

apabullante y tangible no es posible invocar el derecho a la tutela judicial efectiva cuando esta se hace irreconocible en un juicio inquisitivo

este juicio de una lectura política cuando precisamente si algo ha demostrado es que la justicia se ha adentrado largamente en el debate político o si se prefiere desde el punto de vista inverso cuando la política

porque desaparecido cualquier atisbo de procedimiento penal de existencia de caso lo único que quedan son acusaciones injustas infundadas porque perpetrado el disparate jurídico no se ha podido y no se ha sabido dar marcha atrás al tribunal a que adopte ya una decisión no en derecho sino política y porque las discusiones que saquemos del debate de hoy en esta cámara

pero algo más porque sobre todo esta iniciativa interpela directamente a la justicia a la democracia al estado de derecho ese que se cita

mantentzen gaituena reclamamos la superación de las medidas las legislaciones los tribunales y las interpretaciones de excepción

justificaría esa excepción si no hay hecho excepcional cómo se puede mantener la reacción excepcional es como si el endurecimiento paulatino y progresivo

y competencias judiciales hubiera venido para quedarse hubiera llegado para perpetuarse para eternizarse entre nosotros y no podemos aceptar esta situación arrancaba mi intervención hablando de la prueba diabólica

debían demostrar que esa vinculación nunca existió en vez de presumirse su inocencia

a determinar que este juicio habla de la inexistencia de un estado de derecho la falta de garantías procesales de su arbitrariedad

en una justicia con mayúsculas una justicia no politizada una justicia ordinaria aplicada por jueces ordinarios por jueces naturales

una justicia por y para los y las ciudadanas vascas esa es la demanda que introducimos mediante la iniciativa presente y esa es la demanda para la que

muchas gracias presidenta dice eh bildu en la justificación de su iniciativa que

de juicios políticos llevados a cabo por la audiencia nacional

lo que ha sufrido este pueblo y no solamente este pueblo sino el conjunto de los ciudadanos españoles principalmente ha sido la existencia y la acción de eta contra la libertad la convivencia y la democracia

y en el conjunto de españa medidas como la ilegalización de batasuna u otras marcas amigas de eta y la actuación

de los diferentes policías y determinadas decisiones judiciales fueron para los demócratas vascos y españoles una bendición no una bendición sino una bendición de los partidos políticos que impulsaron esas decisiones perfectamente justificadas acertadas y justas por lo tanto

ese tipo de medidas judiciales políticas de colaboración internacional de defensa de los principios democráticos fueron medidas que significaron muchísimo para el conjunto de la sociedad vasca y española porque nos protegían

eta y de los servicios auxiliares aquí presentes se dice en esta justificación que algunos pretenden o pretendemos

defender aquello de que todo es eta no todo no es eta lo que pasa es que

este es el asunto unos disparaban y otros explicaban y justificaban los asesinatos esto

unos disparaban y otros justificaban y explicaban esos asesinatos la estrategia político militar que en alguna ocasión ha señalado el señor

unos asesinaban y otros explicaban y justificaban los asesinatos hubo extorsión hubo secuestros y hubo

los hubo están ahí y tiene que hacerse justicia

mujeres y niños jóvenes y ancianos abuelos y nietos trabajadores y parados profesores universitarios

dependientes de tiendas de golosinas guardias civiles

y representantes de los ciudadanos asesinados todos ellos como consecuencia de la acción criminal de eta

dispensó a esa banda terrorista esto sucedió señor

otra historia en euskadi y en españa no se han perseguido planteamientos políticos democráticos y legítimos lo que

perseguir a una banda terrorista y a los que la han sustentado es decir básicamente ustedes de hecho han sido ustedes y los inquisidores de eta quienes han perseguido a determinadas formaciones políticas
y a las personas que la defendían maneiro jauna momentu bat mesedez maneiro jauna

la historia y la importancia de defender el estado de derecho y las decisiones judiciales

esto es lo que estoy básicamente defendiendo y a día de hoy lo cierto es que eh bildu sigue sin condenar la actividad terrorista de eta este es un hecho absolutamente cierto y es cierto que ahora exigen garantías judiciales y respeto a los derechos humanos

y respeto a los derechos civiles y políticos los mismos que aplaudieron determinadas ejecuciones sumarias de inocentes que hoy siguen sin condenar ahora dicen algunos que la ciudadanía anhela ilusión desea contribuir un nuevo futuro en paz y basado en la justicia el respeto el reconocimiento en fin nosotros vamos a defender siempre la aplicación del estado de derecho y de ahí nuestra enmienda defender

esto es lo que nosotros defendemos defender la convivencia y respetar en todo caso las decisiones judiciales eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta buenas tardes señorías buenas tardes a todos y a todas

la prueba diabólica ni le voy a hablar del artículo tres del código civil

ni le voy a hablar del artículo veinticuatro de la constitución española ni le voy a hablar de los principios rectores del proceso penal

es exactamente y de manera telegráfica una serie de puntualizaciones para poner algunos puntos sobre algunas ies primera cuestión

este debate que nos plantea eh bildu en esta ocasión ya empieza a aburrir a las ovejas

de confrontación de dialéctica política y con todo el respeto a todos los grupos de esta cámara y a todas las personas que puedan estar aquí pero empieza a aburrir

las vicisitudes judiciales que puedan tener eta quien en su momento no han pertenecido a eta pero ha jaleado quienes han justificado sus crímenes quienes

de alguna manera no han hecho las cosas como debieran

no son un problema de la sociedad vasca segunda cuestión en términos estrictos

de respeto a las posiciones políticas y no solamente de respeto a las posiciones políticas sino de respeto

otro debería estar desde luego mi grupo no lo está en condiciones de afirmar

implicados como acusados en este proceso forman en este sumario forman o no parte de eta eso será la justicia quien lo diga quien lo afirma quien lo niega o quien lo matice tercera cuestión

que ser la verdad judicial de este asunto en este país nos conocemos todos todos sabemos a qué ha estado jugando cada uno y por tanto parece bastante dudoso pensar que las herriko tabernas fueran una correa de transmisión por ejemplo del partido socialista cuarta cuestión

clara e inequívoca de rechazo a la organización terrorista que ha sembrado este país de muertos en defensa de un proyecto totalitario y hasta el momento no hemos visto

quinta cuestión eta se va pero la democracia y las instituciones democráticas se quedan y eh bildu

ha pasado a ser un partido constitucionalista por eso están ustedes aquí en este parlamento

asumiendo la legalidad toda la legalidad incluyendo la ley del partido una ley que

fue avalada por ese tribunal europeo de derechos humanos al que tanto valor le damos a veces y que lo reconoció como una ley necesaria para defender la democracia a la vista de los resultados que ha producido que ustedes puedan estar aquí parece que fue mano de santo porque entre otras cosas

se supone que eta está donde está es decir no va volver a actuar sexta cuestión que complementa la anterior ustedes los parlamentarios de bildu pueden

en virtud de decisiones tomadas exclusivamente según ustedes por motivos políticos y nosotros afirmamos que esas decisiones las tomó la justicia en cumplimiento de la legalidad vigente de acuerdo con una autonomía que les expropian en función de la separación de poderes del estado que como

todos que respetar ustedes también de la misma manera que de hecho

sus propios estatutos asumieron la legalidad constitucional y la ley de partidos

las decisiones de la justicia señores del eh bildu y también señores del pnv hay que respetarlas siempre las decisiones firmes hay que respetarlas

porque esos son las reglas que nos hemos dado todos y son las reglas del juego por lo tanto y cuando digo firmes y eso es lo que se recoge

respetarlas cuando no son firmes se pueden apelar se pueden recurrir

pero siendo firmes hay que respetarlas uno puede estar de acuerdo o no pero el respeto va de suyo

exigibles en democracia que cuando los legalizan por considerar que estos requisitos se cumplen por eso y digo el me refiero al partido nacionalista vasco porque hay un ese comunicado del ebb que no tiene desperdicio

que no son compatibles con una trayectoria democrática sostenida por todo ello los socialistas vamos a votar en contra de esta proposición

pulcra como el agua clara y limpia como el agua pura dice

que si efectivamente todas esas cuestiones en fin burdas y procesales que se hayan podido dar en ese juicio son ciertas la sentencia va a ser absolutoria con seguridad y si no tendrían ustedes

ocasiones también ha sido así y en segundo lugar muestra su absoluto respeto por las resoluciones

de los juzgados y tribunales al tiempo que ratifica con su compromiso con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo veinticuatro de la constitución española y demás garantías reconocidas en la legislación española internacional la

y el derecho de defensa el derecho de defensa el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas que ahí

lo que como no sé es cómo ha ido el sumario cómo ha sido el recorrido sumarial de este asunto

por el uso o el abuso o el uso extenso de los recursos por lo tanto invito a todos aquellos grupos parlamentarios que no han presentando enmienda o que incluso la han presentado
voten esta porque es como digo pulcra y absolutamente impecable gracias eskerrik asko gallastegi andrea

gracias señora presidenta y buenas tardes a todos como dije la semana pasada y voy a comenzar de la misma manera asistimos de nuevo a una ceremonia de la confusión es esta

que eh bildu nos trae a esta cámara pleno

que con lo que buscan es poner en solfa la democracia en españa y su calidad

y de estado democrático pero para poner en duda el mismo

en un estado de derecho en un estado

que es lo que evita aplicaciones de la ley desmesuradas abusivas o arbitrarias disfrutamos afortunadamente de un sistema de contrapesos que garantizan

y sometidos al imperio de la ley y el derecho derecho que tiene su máxima expresión en la constitución que es la base del ordenamiento jurídico

plagado de garantías que defienden y protegen los derechos fundamentales y de ciudadanía de todos de todos y una de esas garantías lo constituye que el derecho penal y por tanto su consecuencia la pena solo puede ser aplicada por los tribunales de justicia

del estado por mucho que usted intente hacernos vender o hacernos ver otra cosa y también yo sí le voy a decir

el derecho a la tutela judicial efectiva para todos para todos y eso lo que supone es una garantía de que toda resolución judicial debe estar fundada en derecho que ningún encausado puede sufrir indefensión de que todos

y si no fuera así el estado tiene mecanismos para combatirlo en españa todos los procesados por muy graves que sean sus delitos mantienen intactos el derecho a la defensa el derecho al tribunal imparcial el derecho

y por supuesto el derecho a la presunción de inocencia

hacer esta introducción de pequeños fundamentos jurídicos porque usted ha intentado basar

pero no es así usted lo que ha hecho en realidad es

sobre nuestro sistema legal para contrarrestar lo que decía al principio de esa ceremonia de la confusión en la que ustedes pretenden

organizada y orquestada en la que no solamente durante muchos plenos

la sombra de la duda sobre la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado también sobre el gobierno y esa duda quieren extenderla también y lo hacen hoy aquí

de justicia sobre la actuación de los tribunales la estrategia es mucho más de fondo y lo que pretenden es desacreditar como siempre lo han hecho al conjunto del sistema presentando a nuestro país como una democracia de baja calidad sin garantías jurídicas

y ajeno a cualquier principio democrático y no lo es

y ha habido encausados que han sido excluidos de este proceso que se está realizando

y no lo es por mucho que ustedes ahora aquí digan una y otra vez que no existen garantías jurídicas

que la democracia ha cosechado en la lucha contra eta ha sido fruto de investigaciones laboriosas realizadas

y por los tribunales de justicia española es cierto que estamos en un nuevo tiempo pero yo le he dicho muchas veces aquí que no estamos en el tiempo por mucho que ustedes se empeñen no estamos en el tiempo es verdad que eta ha anunciado el cese de la actividad terrorista

no se ha disuelto ni ha entregado las armas ni ha renegado ni muchísimo menos de su pasado la decisión de eta además de abandonar su actividad terrorista no ha surgido de forma unilateral

no porque hayan llegado a un proceso de reflexión ética si ha decidido

ha sido por una reflexión estratégica ante la derrota de los poderes del estado

y conseguida bajo la convicción de que la lucha contra el terrorismo exigía una visión y una actuación mucho más amplia que la detención de los comandos usted aquí ha hablado de que todo es eta

todo no es eta pero eta es mucho más que los comandos muchísimo más

vasco eran ejercidas a través de distintas fuentes de distintos medios de actividades complementarias y estrategias llevadas a cabo por distintas

hay que recordar aquí un argumento y una expresión que hemos utilizado en otras ocasiones y es que eta ha demostrado ser un holding criminal

muy concreta pero todas iban dirigidas al mismo objetivo al mismo que no era otro que la ruptura del marco de convivencia y el desbordamiento del marco jurídico

que ha quedado refrendado por las autoridades judiciales europeas la ley de partido ha sido el principal instrumento para afrontar la derrota de eta en todos sus frentes

por las instancias judiciales europeas el tribunal europeo de derechos humanos ese que aquí ustedes en muchos plenos han loado como un tribunal mucho más ecuánime que las instancias judiciales españolas

expresaba que las ilegalizaciones tenían como objetivo mantener la seguridad jurídica la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos expresaban

y expresó que la ley de partidos no estaba destinada a prohibir la defensa de ideas o doctrinas

y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia y es más

era una necesidad social imperiosa por lo tanto las instancias judiciales europeas

efusiva las decisiones adoptadas por los poderes del estado en la lucha contra el terrorismo refrendando las convicciones políticas que algunos hemos defendido siempre a veces en solitario

a las declaraciones en las intervenciones realizadas que lo que pretenden es inocular en la ciudadanía una imagen totalmente tergiversada y distorsionada en nuestro sistema de garantías

pretenden instaurar esa teoría del empate infinito tratando en muchas ocasiones de invertir los roles entre víctimas y verdugos

tratando de condicionar la imparcialidad del de venir en el proceso penal y termino como he empezado señor arzuaga ustedes pretenden aquí pleno tras pleno

instaurarnos en la ceremonia de la confusión y desde el grupo popular desde luego no van a encontrar ninguna colaboración para hacerlo nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

honetara pasa behar dut señor maneiro dice que la ilegalización las condenas las medidas judiciales fueron una bendición

no se ubica en este nuevo escenario en este nuevo tiempo habla de lo que

en el pasado lo malo es que en el presente lo hay y todavía sigue sucediendo vulneraciones de derechos en este caso de derechos procesales del derecho

más me ha sorprendido que la señora gallastegui en cierta manera coincidiese en este argumento con el señor maneiro al decir

en algunos juicios penales lo que conllevaba es tener un efecto allá y eso me sorprende porque no me parece demasiado apegado a la ley vinculado al derecho penal estricto que usted además normalmente suele manejar se pueden tener otros objetivos pregunto

una pena al iniciar un procedimiento penal se puede tener en mente otros objetivos porque eso tiene un nombre y es perseguir fines espurios tal vez cargando un poco los términos son fines bastardos la señora llanos me dice que son iniciativas para poner

ojalá podría evitar el traer este tipo de iniciativas lo que pasa es que donde usted un sistema plagado de garantías

de excepciones un sistema absolutamente parasitado por reformas por esa técnica de los artículos en bis por esas normas paralelas que lo que hacen no es tratar a algunos ciudadanos concretos como ciudadanos sino tratarlos precisamente como enemigos para poderlos castigar mejor

es un tiempo nuevo pero no es el tiempo y precisamente no es el tiempo por su apego a esa excepción por su apego a mantener las espadas en alto

estos procedimientos penales que son también violencia se nos decía que hay que asumir la justicia y yo pregunto a qué justicia se refieren a la que presuntamente aplica la audiencia nacional es decir a ese

tal vez la que perpetra el tribunal supremo esa dirigida por un conocido y reconocido militante del partido popular tal vez la que sancione o tal vez no

jurídicos ya estamos preocupados por su composición esa que nos llevará al azar a saber si nos va a tocar un tribunal más o menos conservador

que debemos de soltar amarras me sorprende señora gallastegui porque había un argumento

lo han desgranado que es ese de que la justicia se debe de aplicar en base a social cierto que puede ser difícil verificar cuál es la realidad social pero yo creo que hoy en este parlamento se va a hacer un esfuerzo por aclarar por verificar cuál es la realidad social y en base a la cual consideramos que debe de aplicarse la justicia mire se están criminalizando ideas y es eso precisamente lo que nos decían los

la comparecencia en la comisión de derechos humanos se están criminalizando ideas al no haberse podido demostrar ninguna vinculación entre los encausados y la organización eta hay una motivación una intencionalidad que es criminalizar precisamente el debate que se debía dar en la arena política precisamente por eso se lleva a tribunales como ayer a asier arraiz por eso se da la interposición

del anterior del anterior de la mesa de este parlamento al tribunal europeo de derechos humanos porque se violaron estos derechos procesales o por eso se ha sometido a pena del banquillo a tantos y tantos lideres políticos algunos de los cuales todavía están aquí presentes y seguramente lo tendrán

exacerbadas expansivas e injustificadas ninguna decisión

puede ser aceptable si no es la de la absolución ninguna decisión de continuar por la pendiente resbaladiza de estos juicios penales puede ser aceptable

su cinismo político sus mentiras o incluso sus insultos un tal patxi bengoa

fotografía a este parlamentario mientras hace uso de su libertad de expresión para insultarle fascista esta es la forma de actuar

insultar fascista a un parlamentario únicamente por defender el estado de derecho defender la democracia defender la independencia judicial

y recordar los hechos ocurridos que ha sido básicamente lo que este parlamentario ha hecho y ciertamente sigo sin entender cómo se me ha quitado

por hacer un análisis de las cosas que estos señores que eh bildu han planteado en su iniciativa y en concreto en su justificación que es lo que yo

entrase en el debate sobre esto es sobre lo que yo estaba hablando y se me ha quitado el uso de la palabra se me ha dicho que no continuara por ese camino

llama fascista a este parlamentario en esas estamos yo señora presidenta exijo que se expulse a esa persona que está ahí arriba que está

a este parlamentario es absolutamente inaceptable es eh bildu quien plantea permanentemente estos debates

a exponer cuáles son nuestras opiniones hasta ahí podíamos llegar son ellos los que traen permanentemente estos debates

vamos a seguir haciendo uso de la palabra y yo lo que yo he hecho es

cuando se dice sin ir más lejos que este pueblo ha sufrido durante mucho tiempo una sucesión de juicios políticos y yo he dicho que lo que este pueblo ha sufrido básicamente ha sido la extorsión la amenaza y los asesinatos de eta que estos señores

siguen sin condenar esto es lo que yo he dicho y he recordado los hechos obviamente hubo extorsión hubo secuestros y hubo asesinatos y efectivamente sigue viva una banda terrorista que ustedes no han condenado

y es presente no sé si la presidenta va a expulsar a la persona que está arriba ha insultado a este parlamentario yo en todo caso quiero terminar diciendo que eh bildu quiere ahora parar los juicios

tiene todo el sentido del mundo nuestra enmienda defender y revindicar la aplicación del estado de derecho

para lograr la derrota definitiva e incondicional de la banda terrorista eta e impedir que pueda producirse ningún tipo de impunidad una enmienda perfectamente

al parecer el partido nacionalista vasco vuelve a echarse en brazos de eh bildu y evidentemente es una muy mala noticia para la convivencia en euskadi

creo que tenemos una relación respetuosa además hablamos muchas veces en los mismo términos y

podemos entendernos entonces creo entender que por lo tanto ha tenido que haber una confusión porque yo no he bendecido ninguna modificación

condenar cosas he dicho que era mano de santo concretamente mano de santo la ley de partidos políticos porque provocó lo que provocó y no debe ser tan mala para ustedes ni tampoco la constitución voy a leer textualmente

la nueva formación política que se constituye con forme al canon de legalidad ordinaria y constitucional configurado por el artículo seis de la constitución española la ley orgánica

y del tribunal constitucional que los han interpretado este es el capítulo preliminar párrafo cuatro de los estatutos de sortu luego quiero decir

el tema del artículo tres del código civil eso de la aplicación de las normas que conforme al tiempo en el que se tienen que hacer

y las normas penales y procesales penales no son disponibles

en relación con la interpretación de las normas es que se interpretarán en el sentido propio

y la realidad social pero no es disponible el código penal de la misma manera que no le es disponible para decidir que lo que antes era una violación ahora va a dejar de ser una violación por ejemplo

decir usted sabe igual que yo porque es usted es jurista que no se puede disponer y además

y es que esa equidad que ha de ponderarse en la aplicación de las normas

solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permite que es algo que no pasa

el proceso dilatado en el tiempo también es causa la audiencia nacional

es un tribunal ordinario predeterminado por la ley y así lo ha reconocido exactamente la comisión

digan ustedes lo que digan en aquel caso famoso de barbera y además ustedes saben perfectamente que no contraviene para nada el

de la constitución sobre el derecho al juez predeterminado no natural que esa es otra cuestión también podemos discutir de eso

en otros momentos yo señora arrizabalaga yo con todo el respeto

defender la posición sobre todo mediática de su partido

en otras ocasiones pero hay cosas que en fin usted cómo sabe que este sumario es un despropósito está personado en este sumario el ebb está personada usted

y por eso decía que mano de santo vamos a recordar a san prudencio que viene enseguida

si lo es porque en su momento no se procedía al archivo o no se procedió al sobreseimiento que me imagino

ya veremos qué es lo que pasa pero decir que esto es un despropósito oiga no

que la justicia penal siempre ha preferido un culpable en la calle

y eso es un principio del derecho penal porque saben ustedes exactamente que condenar a un inocente es como decapitar a la justicia con su propia espada y eso en términos democráticos
es admisible gracias eskerrik asko gallastegui andrea

gracias de nuevo señora presidenta gracias por dar la palabra a una demócrata de toda la vida y lo digo porque es lo que están poniendo quienes están ahí que están fotografiando las intervenciones y en un ejercicio de aquello que tanto proclaman

y de la pluralidad y de las posiciones políticas de los demás pues la calificación es una demócrata de toda la vida yo sí soy una demócrata sí soy una demócrata

pueden llevar ese apelativo pero yo sí

otros se metieron para dinamitarla pero en fin se hablaba

en la iniciativa de aplicación de la legislación ordinaria

para el terrorismo que quien asesina quien extorsiona quien secuestra pero además lo hace perteneciendo a una banda terrorista tiene un plus

porque los delitos de terrorismo tiene un plus porque intentan socavar el estado de derecho ese estado de derecho que ustedes aquí han puesto en defensa pero en el que no creen

o por lo menos tienen una concepción del estado de derecho que creo que ningún demócrata compartiría y dicen que cuál es nuestro apego

y nosotros claro que queremos que eta acabe claro que queremos los primeros los que más

para que acabe ni se le pagaba cuando mataba ni se le va a pagar porque deje de matar no no la disolución tiene que ser incondicional de la misma forma que estratégicamente el cese de su actividad armada porque estaba derrotada y esa derrota se ha conseguido por una victoria del estado de derecho entre otras cosas por la ley de partidos esa ley que ustedes al menos de facto y en sus estatutos han tenido que hacer una serie de declaraciones nunca lo que no acaban de hacer y a pesar de que se los exigimos una y otra vez aquí

condenar el pasado de eta y pedir a eta que se disuelva eso no lo acaban de hacer y eso por lo visto debe de ser muy propio del estado de derecho y del estado democrático

triste me parece una regresión pero es que esa regresión suya ustedes también cuando el diez de octubre del dos mil trece tienen que hacer una declaración sobre lo que les parece este juicio

que son cuando menos osadas se lo decía además la señora gallastegui dicen que el proceso carece de toda base jurídica será que ustedes están personados y han

todo el sumario y son capaces ustedes de decir que carece de una base jurídica total y absoluta ya dicen cómo debe finalizar eso no es ingerencia eso es respeto a la separación de poderes total que en que debe finalizar

con la absolución porque otro fin sería

al avance del proceso de paz y la normalización política en euskadi es decir que las resoluciones judiciales

en función de una determinada finalidad extraño concepto de la justicia

se lo daban en la mía desde luego ese concepto de justicia a mí jamás me lo explicaron la justicia es justicia y desde luego

no tienen que hacerse las resoluciones para que coadyuven a no sé que determinadas

detenciones de etarras que ustedes las han cuestionado y las han cuestionado exclusivamente porque ustedes consideraban que perturbaban el proceso de paz ustedes estaban pidiendo

para delincuentes porque suponían una perturbación para el proceso de paz ya les digo una curiosa forma de entender la justicia y el estado de derecho nosotros no la compartimos en absoluto y yo solo les digo de verdad

a esa separación de bildu de verdad que lo demócrata no es precisamente tener

dugulako egia esan estado de derecho arriba y abajo yo

estudie iba a decir asistí a la misma facultad que la señora llanos

hay una sentencia del año dos mil seis de cuando a un pobre hombre le acusaron de ser el talibán español yo la verdad es que no me acuerdo de él pero por la referencias que hay en internet debió de ser muy famosa el tribunal supremo

con iniciativas caracterizadas por la vulneración de los valores que se dicen defender el derecho penal del enemigo vendría a ser más propiamente la negación del derecho penal en la medida que trata de desposeer a sus propios destinatarios de algo

su condición de ciudadanos que es lo que he pretendido decir antes la condición de ciudadano no es algo que en base a circunstancias políticas o de otra índole en base a gustos personales o valoraciones de alguien aunque sea juez se da o se quita sino que es algo que

y en base a ese reconocimiento establece cuáles son las garantías que hay que aplicar a ese ciudadano incluso aunque ese ciudadano no solamente sea acusado sino que sea condenado después de las pruebas y de los procedimientos oportunos por

es un estado social y de derecho no es un estado de derecho algo simplemente porque se invoque su nombre sino porque se cumplan sus principios

nulo o relativo respeto hacia ellas claro que nosotros respetamos los poderes

si se hubiera dado una vuelta durante estos últimos años por el estado español en más de una ocasión hubiera quedado ojoplático por la forma

y no desde luego por nosotros creo que en muchas más de una ocasión por los propios poderes del estado en cuanto a los principios del artículo veinticuatro

de poderes no por eso deja de tener un mínimo de lógica o de raciocinio en sus valoraciones pues nos da que no se garantizan

mínimamente esas garantías procesales en realidad yo confío en que cuando el tribunal tenga que dictar

si es que nadie toma la decisión que nos parecería mucho más adecuada jurídicamente mucho más adecuada

esa sentencia sea absolutoria en fin es que lo contrario sería realmente esa sí que sería realmente grave y además seguramente avocaría de nuevo el conducto

al estado español aunque solo sea por estética tampoco le interesa eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaidak amaituta